zuten y esta misma semana el lunes se ha firmado en el marco de colaboración coordinación y acuerdo

como lehendakari con tanto tesón está usted impulsando se ha concretado este nuevo acuerdo un acuerdo interinstitucional entre el gobierno vasco

para el desarrollo de actuaciones de reactivación económica y proyectos de inversión con cargo

eta markatu egin behar du gainera mi valoración por lo tanto señora gorospe es positiva pero me parece más relevante que el hecho de que la valoración sea positiva señalar que esta valoración positiva ha sido suscrita también por tres diputados generales

representamos a cuatro instituciones diferentes y pertenecemos a tres partidos políticos distintos el hecho de que compartamos una intención una visión y una actuación que usted ha subrayado es relevante pero es nuevo y es positivo

a un sentido político además del objetivo de reactivación económica obedece a un sentido político como es el de extender una nueva cultura del acuerdo en euskadi creo que la sociedad vasca la merece es un primer paso y nos marca el camino a seguir

el día a día mediático el día a día en la opinión pública

las propicia la sociedad nos está demandando concertación y creo que este acuerdo es un ejemplo de ello la sociedad nos está demandando que prioricemos la reactivación económica y la creación de empleo y creo que este acuerdo responde a ese objetivo y este acuerdo por lo tanto responde a una demanda social es suficiente

pues no no es suficiente porque la sociedad nos demanda

empeñado este gobierno y ahora tenemos también una oportunidad para el acuerdo las cuatro instituciones firmantes gobernamos en minoría y esto hay que reconocerlo

es necesaria la estabilidad institucional y creo que este acuerdo puede dar pie a lo que pueda ser también el desarrollo del ejercicio del debate de los proyectos presupuestarios

la estabilidad institucional y presupuestaria en un año que viene que va a ser también difícil eskerrik asko

ezinbestekoa dela y la crisis deja también en evidencia que el tan nombrado autogobierno parece ser que no sirve para dar una salida social

a miles de personas sean trabajadores públicos o no que nada han tenido que ver y esto es importante con el origen de esta crisis y que son quienes están pagando esta crisis

para que proceda con arreglo a lo establecido en la ley a ver si existen responsabilidades penales hori hor dagoigual que las banderas exactamente igual que en el tema de las banderas

los cambios curriculares deben ser razonados y fundamentados

y no en la difusión de la ideología de quien gobierne bien estoy de acuerdo con esta afirmación pero quién ha dicho de dónde ha sacado que los cambios curriculares que puedan realizarse no vayan a ser razonados y fundamentados en una entrevista reciente señala

esas fueron sus palabras señora celaá vamos a ver en qué se basa para

cómo puede llegar a semejantes conclusiones basándose en una propuesta de trabajo

una propuesta de planificación y unas ideas básicas sobre las que empezar a trabajar eso es lo que recoge el documento marko horrek har dezakeen itxura

usted bien sabe que tras reunirme con los agentes educativos el mismo dieciocho de septiembre solicité de inmediato comparecer en comisión para explicar los pormenores de esta iniciativa

era y es dar a conocer esta iniciativa a todos ustedes acordamos que la comisión tendrá lugar el catorce de octubre hala ere elkarrizketa horretan

por querer españolizar cataluña con qué autoridad censuraríamos el contenido de la ley wert por sus infiltraciones

y del nacional catolicismo que efectivamente está introduciendo en la ley con qué autoridad lo haríamos

de llevarse a cabo ese proyecto esa propuesta que nos ha llegado está abordando una operación política con objetivos políticos utilizando

del sistema educativo vasco y le voy a decir por qué usted tiene como objetivo de su propuesta

y para usted el suelo común es la unificación de todos los curricula de los territorios de euskal herria con un afán expansionista

usted va a tratar de plantear su propuesta desde no sabemos qué competencia a las competencias no solo de navarra sino del estado francés

está el de acercar la realidad de la identidad del pueblo vasco con objetivos étnicos y culturales

desde qué ideología puede dictarse eso desde una que nosotros no compartimos porque usted ha de ser consciente de que está trabajando en una

que es plural intercultural cuyas personas se sienten con identidades múltiples y que desde luego somos nacionalistas no nacionalistas somos tirios troyanos y hasta laicos desde una perspectiva política en dos mil trece ningún sistema educativo que se precie ha de ser

por qué porque también esto tiene una razón por qué porque ningún alumna ha de sentirse desigual dentro del sistema educativo para eso ya tiene la concertada con religiones concesionales o ya tiene ikastolas pero la educación pública ha de ser aquella que prepare condiciones

no pierda usted el tiempo en todos esos meandros y disquisiciones étnicas si el sistema educativo vasco tiene muchísimo trabajo por delante

pero desde luego no es excelente tiene que abordar la tarea de la excelencia tiene que abordar la tarea de las ciencias y desde luego tiene que perseguir con mucho más impulso

lo que tiene entre manos es decir el bilingüismo

más inglés más inglés desde luego las nuevas tecnologías la formación profesional con mucho más impulso con mucho más entusiasmo así que señora usted tiene
un amplio campo que labrar desde la eskerrik asko celaá anderea amaitu da denbora

señora celaá hay ciertos aspectos que no puedo permitir y no puedo permitir que

como bien sabe la comunidad educativa ha planteado en numerosas ocasiones la necesidad de consolidar un sistema que garantice la mejora educativa y la defensa del currículo vasco una que este gobierno recoge por ello lo introdujimos en nuestro programa de gobierno no es una invención nueva señora celaá página ciento doce objetivos tres y ocho laburtuz honela dio

horretan ari gara hezkuntzako eragile guztiekin eta haiek asko eskertu digute estamos trabajando de la mano de los agentes educativos

sino con todos los agentes con independencia de su ideología con independencia de su posición

ezin gara begira geratu por ello presentamos una planificación que nos llevará a construir un sistema educativo unificado en la comunidad autónoma del país vasco y lo haremos no tenga ninguna duda con consenso o cuenta con el adecuado consenso

un sistema basado en los principios de equidad y eficacia que respete la identidad y el carácter propio de los centros públicos y concertados

lehendakari convendrá conmigo con que hay asuntos realmente importantes asuntos que son importantes para euskadi

preservarlos y usted cree que fortalece a euskadi sostener públicamente que el debate del concierto económico ni más ni menos surge para evitar el de autodeterminación usted cree que es bueno que los vascos para los vascos decir

usted cree que es bueno para el concierto y para los vascos apelar a los tanques a que salgan los tanques

es inamovible creo que usted como lehendakari tiene una responsabilidad enorme para preservar lo fundamental y lo fundamental creo que compartimos lehendakari que es el concierto creo que ya está bien de que su partido tensione innecesariamente nuestra sociedad con enfrentamientos ficticios

autogobierno y me gustaría recordarle una cosa el concierto económico no es una reclamación de origen nacionalista y ustedes lo saben sino foralista

lo defendemos aquí en españa y en europa no jugamos con él lo usamos con responsabilidad y no amenazamos y le pedimos a ustedes que hagan

lehendakari cree usted que este tipo de declaraciones de compañeros suyos de partido elevando la tensión se ajustan a la realidad y

me llama la atención que me pregunte a mí sobre declaraciones de otros dirigentes políticos e institucionales y no sé

ni yo he dicho ni los consejeros de este gobierno han dicho se lo digo con absoluta franqueza no sé si es correcto que yo responda y entre

me hace una pregunta a mí utilizando declaraciones de otros y sinceramente

y de las mías propias usted no ha podido utilizar por lo tanto una declaración mía porque de forma permanente trato de encauzar el acuerdo desde el entendimiento desde el diálogo desde la negociación y usted lo sabe señora quiroga

sino que lo hago por convicción y lo he dicho antes en la primera pregunta a la que he dado respuesta en la sesión de esta mañana y así lo voy a seguir haciendo

el fondo de la cuestión es importante como usted plantea le voy a responder con una sola palabra

décimos lo mismo el concierto económico establece una relación bilateral entre euskadi y el estado

requiere un respeto y requiere un reconocimiento mutuo no se estaba respetando esta bilateralidad ni con este gobierno vasco

apoyaban espero que la disposición permanente que en todos y todas las consejeras de este gobierno para la relación institucional también

en las aportaciones que está realizando para

la negociación de la concertación de tributos de la liquidación del cupo

espero que tengan la respuesta recíproca por parte del gobierno español en ese concepto de bilateralidad que es la característica del concierto económico y que se respete por lo tanto lo que es

estoy de acuerdo bilateralidad lealtad y no tendré que recordarle porque seguro que usted lo sabe que el cálculo del cupo se realiza de acuerdo con lo establecido en la ley del concierto donde no hay cabida

créditos unilateralmente devengados si eso lo saben perfectamente por qué pretenden transmitir la idea de que el estado

ingentes cantidades de dinero dicen que eso supone un castigo político social y financiero del gobierno español al conjunto de la sociedad vasca

de su partido del partido que sustenta a este gobierno

determinadas declaraciones como las que yo he expuesto aquí me doy cuenta de que están ustedes llenos de viejas ideas de viejos clichés

dicen hablar al ciudadano como si fuera menor de edad alguien que necesita ser guiado

en la discusión la pasión en la discrepancia está bien pero el respeto

atender a la realidad y responder ante ella estamos tan enfrentados en el titular que dejamos de lado la reflexión

al discrepante que no buscamos sus razones y sus aciertos oigo mucho eso de acuerdo entre diferentes cuando lo primero que deberíamos es recuperar el respeto entre diferentes

respetada y esto sin duda ayudaría mucho a la gobernabilidad a su desarrollo y a su progreso porque los debates desde el respeto son los que se escuchan y son los que cambian las cosas por eso lehendakari creo que con declaraciones como la que yo le he relatado aquí creo que no le señalo y que no contribuyen para nada a algo bueno

creo que tensionando y le pregunto si tensionando cree que va a conseguir esos

señora quiroga me ha escuchado usted alguna palabra de tensionamiento

en relación al concierto económico en relación a la preservación de lo importante

usted pregúnteme a mí por lo que yo o por lo que los consejeros y consejeras

me ha escuchado usted alguna palabra de tensionamiento en una disposición permanente al diálogo a la negociación al acuerdo también con el gobierno español en una situación en la que hemos vivido durante los meses de julio y agosto

señora quiroga usted ha dicho asuntos importantes y preservar lo fundamental a eso voy no le pido declaraciones de apoyo al concierto económico yo le pido hechos y actuaciones en su papel como presidenta del partido popular del país vasco ante el partido popular español

pero tampoco conseguía avanzar en el acuerdo y ustedes eran socios de gobierno apoyando desde el parlamento al gobierno anterior el problema es más de fondo el problema radica en el respeto a una relación bilateral singular y al gobierno español a los gobiernos españoles

y si la bilateralidad se acepta estamos fomentando el acuerdo señora quiroga si la bilateralidad se acepta si se trata de imponer

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos señor

consejeros yo la pregunta que quería realizar al propio lehendakari al propio gobierno vasco y en concreto en esta ocasión a la consejera de seguridad si está el gobierno todo lo que puede todo lo que debería para luchar contra la corrupción si están los poderes públicos haciendo todo lo que pueden o todo lo que deberían para luchar contra la corrupción y si podrían hacer más y qué más podrían hacer

consejera de seguridad está su departamento haciendo todo lo que puede todo lo que se le pide para luchar contra la corrupción en nuestra opinión

ha denunciado la falta de medios con los que cuenta la justicia para luchar contra la corrupción los fiscales señalan que la escasez de medios puede generar impunidad

es descorazonadora se habla de medios escasos o incluso inexistentes se habla de precariedad de medios materiales y humanos

en ocasiones una tarea poco menos que titánica para luchar contra la corrupción se habla de procesos que se alargan en el tiempo que no se cierran todo esto provoca impunidad y en nuestra opinión esto es algo absolutamente inaceptable ya en febrero el fiscal superior pidió más medios para luchar

los fiscales subrayan que algunos de los cuerpos que deben realizar esas pesquisas están controladas por otras instituciones administrativas

y a los partidos políticos en el poder hace un año que el juez y el fiscal del caso de miguel

sobre una serie de movimientos bancarios relacionados con el caso un informe señora consejera que no termina de llegar por qué no termina de llegar este informe qué es lo que está haciendo el gobierno y su departamento para paralizar la investigación de este caso concreto y al parecer asignó un único agente al caso de miguel de ahí que la investigación de cerrarse en fin se plantean quejas se plantean reivindicaciones concretas existe la sensación tenemos la sensación desde de que el gobierno vasco no hace todo lo que puede y debe para luchar contra la corrupción y por lo tanto el gobierno vasco está impulsando una especie de impunidad

qué medidas va a adoptar el gobierno y en concreto su departamento para mejorar los medios que se ponen a disposición de la justicia para luchar contra la corrupción

anderea legebiltzarkideok buenos días señor maneiro

habla usted y alude en su pregunta a varias cuestiones

estamos de acuerdo simplemente recordarle que los medios policiales no son el único aspecto es tan solo uno de los aspectos la preocupación ciudadana en los casos de corrupción y la percepción que pueda existir de cierta impunidad pues sí estamos de acuerdo con usted

la sociedad y habla del número de ertzainas que están especializados en delitos económicos

en delitos económicos están apoyados por

que son especialistas en materia informática y en otras tareas de apoyo por tanto

y está haciendo declaraciones sin ningún tipo de rigor

desde el compromiso ético personal y los objetivos del departamento de seguridad los delitos económicos de fraude evasión o corrupción forman ya parte

por eso al hilo de la reflexión estratégica de la ertzaintza horizonte dos mil dieciséis

vamos a elevar al máximo las funciones de información e investigación objetivo desarrollar una auténtica inteligencia policial eficaz en la persecución implacable de todo tipo de delitos económicos compartimos por supuesto con jueces y fiscales

de estos delitos pero sobre todo compartimos con jueces fiscales ciudadanos y ciudadanas la necesidad urgente de atajar todas las prácticas delictivas que atentan directamente contra los valores de la convivencia eskerrik asko

el asunto o el problema no solo que se afiance la sensación de impunidad en la sociedad como usted ha dicho

sino sobre todo el problema fundamental es que haya impunidad y a día de hoy está habiendo impunidad y el gobierno vasco no está haciendo todo lo que puede para que no haya impunidad

todo lo que puede para que se haga justicia y no está poniendo los medios necesarios para luchar más y mejor contra la corrupción

lo mismo esta es por lo tanto la realidad se habla de situación descorazonadora

de informes que no llegan de casos que se cierran este es el asunto que haya efectivamente impunidad

existe impunidad y su departamento debe entregar ya el informe solicitado en relación
de miguel a qué están ustedes esperando qué es lo que ocurre gracias señora consejera eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andreak dauka hitza

las investigaciones judiciales son eso investigaciones judiciales por tanto es el juez instructor el responsable directo de los operativos policiales que se asignan a una investigación

el sistema funciona con absoluto rigor y transparencia una vez iniciada la investigación los agentes que están asignados solo atienden a los requerimientos del juez

por tanto señor maneiro también le puedo decir que a día de hoy en el departamento de seguridad no hemos recibido de manos de ningún juez ninguna queja en cuanto a retrasos por motivos estrictamente policiales insisto y si usted tiene algún dato

conoce algún dato lo que tiene que hacer es denunciarlo y ya sabe dónde tiene que hacerlo por tanto insisto que el que las investigaciones se prolonguen en el tiempo además es algo que hay que analizar en cada caso

el investigar en qué por qué y en qué se está retrasando e insisto el departamento no ha recibido ninguna

de ningún juez de que haya ningún retraso por motivos estrictamente policiales

el grupo parlamentario socialista ha planteado esta interpelación sobre cuáles son los propósitos del gobierno vasco en relación al desarrollo de políticas de apoyo al comercio minorista en euskadi por varios motivos primero porque los socialistas consideramos que el comercio es un sector frecuentemente olvidado por parte de las administraciones públicas y sin embargo constituye un eje fundamental del tejido productivo también porque los socialistas nos comprometimos desde la acción del gobierno del lehendakari patxi lópez

a impulsar de manera decisiva el modelo de comercio vasco recogido en el plan de adaptación del comercio vasco dos mil quince y que tiene entre sus objetivos lograr un comercio desarrollado

y que vienen a constatar la grave situación en la que se encuentra el comercio minorista en euskadi una durísima realidad que es palpable en nuestras ciudades y pueblos y que se ha manifestado públicamente por el sector desde principios de año y en diversas

y que hoy los datos vuelven a avalar con crudeza y con tozudez señor lehendakari

a precios constantes eliminando el efecto de la inflación cayeron el ocho por ciento en euskadi respecto al mismo mes el año pasado

el segundo mayor descenso de todo el estado donde la caída media de las ventas fue del cuatro coma dos por ciento respecto al mismo mes el año pasado

porque en agosto las ventas en el país vasco bajaron un quince coma cinco por ciento

de julio por tanto una bajada de ventas acumulada en todo lo que llevamos de año de un ocho coma uno por ciento

unos datos especialmente crudos cuando ayer nos desayunábamos con las cifras del paro en septiembre en euskadi y había crecido este en nuestro territorio

que especialmente grave resulta que el segundo mayor incremento del desempleo

con seiscientos sesenta y nueve personas que han perdido su puesto de trabajo y el comercio vasco aporta el doce por ciento del producto interior bruto y genera y sostiene el catorce por ciento del empleo en euskadi integra a cuarenta y tres mil empresas de distribución de las cuales veintiocho mil

y en la consideración evidente que el comercio minorista es base importante y dinamizadora de nuestra economía y fuente tradicional de la creación de empleo en el país vasco

a los presupuestos que su gobierno señor urkullu presentaba a este parlamento

en este sector como era la reducción y la supresión de dotaciones económicas que entendíamos indispensables y fundamentales para la supervivencia del comercio vasco

los propios agentes del sector euskal denda asociaciones y plataformas

del rol activo que tenía que tener el gobierno vasco como agente generador de riqueza una reducción que llamaba especialmente la atención al incardinarse

en unos departamentos el de empleo y políticas sociales que reducía también un veinticinco por ciento sus presupuestos respecto al año dos mil doce y en el departamento de desarrollo económico y competitividad que también

gravísima planteaban ustedes hace unos meses suprimir dotaciones económicas para el impulso y mantenimiento de estructuras que contribuyen a mejorar la competitividad del sector planteaban reducir una red formada por las oficinas de dinamización comercial que se reparten por todo el territorio

en colaboración con las entidades con las asociaciones con las plataformas con las agencias de desarrollo local con los propios ayuntamientos desaparecían las becas de asistencia al comercio

a mejorar la dinamización de ese sector y apoyar la inversión en el mismo

ayudas para la reforma y modernización de establecimientos comerciales sin tener en cuenta que en tres años de aplicación de estos programas el ochenta y seis por ciento de esa inversión se hizo en reformas de locales y el catorce por ciento sirvió para la incorporación tecnológica del comercio

de dinero público que invertíamos en el año dos mil doce el propio sector ponía ocho euros con treinta y cinco céntimos y ante esta coyuntura

que estábamos y estamos comprometidos con el mantenimiento con la consolidación y el desarrollo del programa en materia de comercio recogido en ese plan de adaptación del comercio vasco dos mil quince estamos también comprometidos con el refuerzo del grado de desarrollo profesional del sector

su rentabilidad en el pleno de política general que tuvo lugar en esta cámara hace dos semanas

no haber podido responder a determinadas subvenciones en el ámbito de promoción comercial y marcó la necesidad de una reflexión profunda en la atención

y queremos saber lehendakari cómo piensa dar concreción a ese acuerdo que firmamos el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco que usted sancionó con su firma sobre la reactivación económica y el empleo en lo que respecta al eje b sobre medidas de solidaridad por el empleo cuando en el punto séptimo

se señala un nuevo programa específico y concreto de apoyo a la economía de proximidad dirigido al sector terciario y fundamentalmente al comercio el turismo y la hostelería con especial atención a actividades de relevo generacional y transmisión empresarial así como de revitalización

sobre los propósitos del gobierno vasco en relación al desarrollo de políticas de apoyo al comercio minorista de euskadi muchas gracias eskerrik asko

krisiak eragindako egoeragatik baita en el actual contexto socio económico

a muchísimas tensiones tanto coyunturales pero también estructurales como usted misma comentaba motivadas dentro de otras causas por la propia crisis económica

también por el fuerte descenso de la demanda por la escasez de líneas de financiación sin duda que también afectan al sector comercial pero se producen también en este caso como en el sector industrial o en cualquier otro

cambios tecnológicos en los mismos y también afectan al sector del pequeño comercio en los últimos años que ha provocado

nuevos canales de comercialización se hayan desarrollado se haya producido además una desregulación normativa y el cambio en las pautas de comportamiento de cada uno de nosotros de las personas consumidoras también ha afectado a este sector

en el entramado de euskadi tanto por sus magnitudes económicas como por la importancia social pero también un aspecto que usted no comentaba y que sin duda compartirá por su capacidad de estructurar nuestra vida urbana el pequeño comercio estructura y da vida a nuestra vida urbana y sin duda tenemos que continuar con ello

por una gran atomización al mismo tiempo y por una baja integración empresarial es decir

esa gran atomización y en muchas ocasiones quizá la baja profesionalización del sector

muy complicada en estos momentos usted citaba los números la distribución comercial de euskadi

comerciales de las cuales alrededor de veintiocho mil se encuentran en la actividad al por menor la aportación

es decir un número nada desdeñable una aportación nada desdeñable al sector económico en su conjunto genera

es decir un catorce por ciento del empleo como usted mismo citaba y de ese catorce por ciento

si analizamos el dimensionamiento de las empresas esan beharra dago une honetan

askotan autonomo bakarra dute lanean merkataritza horietan las líneas fundamentales de las políticas que hemos venido

las hemos encaminado a través de actuaciones de modernización de las técnicas y medios de comercialización de la reducción de los costes del proceso productivo

que nos conduzcan a tener un mejor conocimiento de las estructuras y los procesos de comercialización es importante destacar que estas políticas repercuten en esa cantidad de personas que hemos dicho ciento treinta y cinco mil y cuarenta y cinco mil empresas pero no solamente a ellas

que acudimos a estos establecimientos en este ejercicio económico de dos mil trece no podemos negar que nos hemos visto condicionados

una serie de prioridades teniendo en cuenta la dificultad y la difícil situación que atraviesa el sector comercial vasco sin embargo hay que decir que este ejercicio se ha visto ligeramente aliviado por una ampliación presupuestaria

y que ha servido para completar alguno de los programas y poner en marcha otros que había sido imposible poner al inicio del año teniendo en cuenta esta situación

para este cuatrienio dos mil trece dos mil dieciséis se han elaborado unos presupuestos que se han orientado especialmente a la inversión en las empresas y el tejido

a su apoyo todos conocemos que debido a esa reducción no ha sido todo lo elevado que se quisiera pero sí se ha enfocado a esos aspectos y se ha pretendido estabilizar el sector que atraviesa ese momento complicado del que hablábamos

el presupuesto persigue y ha perseguido la consecución de un comercio minorista desarrollado eficiente competitivo y profesionalizado

de las personas consumidoras equilibrado en su distribución equilibrado en su accesibilidad territorial

las herramientas que se han mantenido durante este ejercicio dos mil trece y que pretendemos ahondar y profundizar según usted misma comentaba se concretan en cuatro ejes

un comercio competitivo productivo y profesional un comercio que además de sostenerse en el tiempo contribuya a ese tejido económico que pretendemos

es evidente que antes de elaborar políticas debemos conocer hacia dónde las tenemos que encaminar

con la unidad estadística eustat se ha visto reforzada para alcanzar sinergias y disponer de información puntual y adecuada cualitativa y referente que nos permita aprovechar mejor los recursos públicos los escasos recursos públicos de los que disponemos orientándolos a las actuaciones de elaboración de estudios e indicadores

difundiendo la información de la que disponemos para que el comercio pueda adaptarse a esa situación en segundo lugar el eje de la empresa

se ha desarrollado un único programa es cierto

activos tecnológicamente avanzados y favoreciendo la modernización de establecimientos comerciales del sector

y a través de los programas previstos en este ejercicio hemos promocionado un conjunto de actividades que se deben desarrollar por organizaciones empresariales del ámbito municipal con el objetivo de generar alicientes y expectativas de compra a través de animación y dinamización de entornos principalmente urbanos en este momento nos encontramos muy adelantados ya con las tres capitales de euskadi para conseguir revitalizar de forma especial iniciando en esas capitales la actividad urbana y por último el marco

este último eje está orientado a la mejora del asociacionismo comercial en municipios de alta densidad comercial y de nivel de población

a continuación a partir de ahí procederemos a trabajar con municipios de menor densidad de población beraz horiek izan dira eta izango dira lau lerro garrantzitsuak

el gobierno socialista en la anterior legislatura consiguió en un momento duro para el consumo que el empleo acumulado en el sector del comercio creciera más de un cuatro por ciento en tres años

la defensa y potenciación del mismo porque el comercio minorista

y el pasado dieciséis de septiembre el lehendakari conociendo y compartiendo los objetivos y los contenidos del acuerdo firmado entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco para conseguir una euskadi más moderna solidaria sostenible y competitiva se comprometió a desarrollar íntegramente los contenidos del mismo en lo que se refiere a los ámbitos de competencia del gobierno vasco

a defender y desarrollar en los órganos donde el gobierno tiene representación las iniciativas necesarias para el pleno cumplimiento de ese acuerdo y la política seguida por el actual gobierno en materia de comercio nos ha resultado llamativa en este duro escenario de crisis que estamos viviendo porque consejera cuanto mayor está siendo la envestida de la crisis en este sector el gobierno en el que está usted y en el que preside el señor urkullu plantea como receta la reducción

que se venían ofreciendo como importante apoyo a la modernización de establecimientos comerciales y también se producía una fortísima reducción

y hoy queríamos saber en qué se iban a concretar esa reflexión profunda de la que nos hablaba el lehendakari en el debate de política general

el papel que debe jugar el comercio vasco en la recuperación de nuestra economía y si creía que la recuperación del comercio juega algún papel relevante económica general de euskadi porque si lo cree así queríamos saber cómo iba a obrar en consecuencia cómo pensaba actuar para que euskadi dejase de ocupar ese primer puesto en el ranking español del mayor descenso en ventas del comercio minorista

nos ha hablado de un plan de acción de cuatro ejes y a mí me parece

el comercio minorista y el comercio en euskadi en general y hace unos

proposición no de ley que por avatares políticos no va a llegar a esta cámara en la cual planteábamos

de modernización de los establecimientos comerciales proponíamos incentivar las estrategias zonales de cooperación dinamización

dos mil doce pretendíamos desarrollar un programa o plan concreto para que el fomento del empleo en el sector comercial

como un plan de activación económica en este parlamento porque entendemos que la situación es grave porque no valen patrones ya realizados porque hay que hacer un especial hincapié y atender a esas necesidades cuando suponen

vasco lo hemos dicho antes genera y mantiene el catorce por ciento del empleo en el país vasco y es un doce por ciento del producto interior bruto por tanto cifras que no todos los sectores económicos en euskadi pueden plantear por eso es necesario que el gobierno vasco aclare con prontitud cuáles son esas políticas de apoyo al comercio minorista

a tantos comerciantes angustiados por el futuro de sus negocios y por el futuro de sus empleos

pasar del dicho al hecho y promover acciones que lleven al comercio a seguir siendo un sector tan importante como lo es hoy en día en la economía vasca y no

en lo que es el descenso de ventas en españa muchísimas gracias consejero eskerrik asko corcuera andrea

señora corcuera precisamente porque no valen los patrones ya realizados nos hemos dedicado precisamente a elaborar

que no son quizá los más significativos económicamente pero que creo que pueden citar o pueden reflejar

nuestra actuación la que ha sido este año y la que va a ser a continuación en el primero de los ejes en el de conocimiento y personas parece algo no excesivamente importante pero sin embargo lo consideramos crucial con el objeto de atender hacía dónde deben ir nuestras políticas sin conocimiento de lo que está ocurriendo es imposible dirigirlo

y puesto en funcionamiento el dispositivo de observación ikusmer

se han puesto becas de formación para asesores técnicos de comercio con objeto de una vez analizada la situación por este observatorio emprender actuaciones en consecuencia por un valor de cuatrocientos treinta mil euros las oficinas de dinamización comercial

y existe además un servicio de coordinación de las oficinas de

es decir todo lo que supone un soporte a las actuaciones a llevar a cabo las detectadas desde ikusmer

entendemos que un aspecto crucial es la profesionalización del sector no solamente además en comercio sino que en hostelería y turismo

actuación en muchas ocasiones se pierde empleo desaparecen nuestros comercios porque quizá no están bien adaptados a las necesidades y la profesionalización

por tanto necesitamos desde luego emprender esa acción y ahí nos vamos a empeñar a partir del próximo año pero entre tanto en esta línea

de la que se dotó el gobierno vasco de la línea de financiación de circulante de esos trescientos millónes de euros que han sido ya puestos a disposición veinte de ellos se dedican al sector comercial de forma directa para las necesidades del sector comercial en cuanto a modernización de establecimientos comerciales se ha dotado una partida de dos millónes

euros y se han puesto en marcha planes renove de acuerdo y en colaboración con el ente vasco de la energía que han permitido también dinamizar ese comercio en electrodomésticos con un millón trescientos mil euros en ventanas

calderas domésticas dotado con otros cuatrocientos mil euros por tanto ahí también hemos

pero sin duda el plan más importante en este eje que pretendemos que ya se está empezando a elaborar y desde luego en dos mil catorce estará en marcha es el plan de relevo generacional

relevo familiar o que no existen personas interesadas vamos a trabajar porque esos comercios continúen en nuestras ciudades en cuanto a la línea de territorio tenemos una única línea hemos comentado un único programa

y en cuanto al marco institucional señalaría tres líneas fundamentales

proyectos comerciales en áreas de baja densidad es decir por una parte capitales con mayor densidad y por otra parte

y no me gustaría olvidar el recurso presentado ante el tribunal constitucional sobre el real decreto de horarios comerciales festivos

porque creemos además que es una manera de defender el sector haciendo que ellos estén

trabajado de forma muy directa y de la mano con el sector para presentar este recurso y hacer que ellos se sientan cómodos en el marco legal en el que se encuentran en este momento y desde luego no tenga la menor duda de que no solamente vamos a defender el empleo en este sector sino en todos los sectores de nuestra actividad económica porque entendemos que la forma

en todos y cada uno de los sectores comercio turismo sin duda

agrario pesquero y demás todos los que están recogidos en nuestro departamento van a ser considerados de la misma manera no tenga usted la más mínima duda eskerrik asko

señor lehendakari el pasado jueves el día diecinueve de septiembre usted se refirió

que defiende para euskadi pero efectivamente no lo concretó en dicha intervención usted no quiso concretar cuál es su propuesta de nuevo estatus y dejó el debate en manos de los partidos políticos a través de la correspondiente ponencia parlamentaria

a la pluralidad y que su elaboración debería estar regida por el principio de rigor jurídico pero no concretó qué es lo que usted defiende no quiso concretarlo a pesar de que expresamente se le preguntó por ello yo mismo le pregunté a usted que definiera que explicara cuál es su proyecto de nuevo estatus político para euskadi que no quería explicarlo que no quería concretarlo que no quería contaminar el debate que no quería dividir a la población y que por lo tanto que dejaba

ese asunto pero insisto usted dijo que no quería contaminar el debate y que no quería dividir a la población a pesar de que se le preguntó por este nuevo estatus para que concretara

un día después en una entrevista concedida en euskera a la radio pública vasca

el modelo escocés que exista un pacto entre el estado español y euskadi sobre el derecho a decidir que se celebre una consulta en esta legislatura

con una euskadi reconocida a nivel internacional entre otras cuestiones es decir

concretó muchísimo más que en sede parlamentaria qué es lo que usted quiere y es lo que a nosotros efectivamente nos ha llamado

es decir usted planteó en la entrevista ideas y propuestas que evitó y ocultó durante su intervención parlamentaria del día anterior y por lo tanto consideramos que es una falta de respeto y que en todo caso es absolutamente paradójico que usted

defiende porque dice que no quiere contaminar el debate ni dividir a la población y al día siguiente concrete muchísimo más ese modelo

yo le quiero preguntar cuáles son sus verdaderas intenciones en relación

y no tengamos que escucharle a usted este tipo de cuestiones

otras radios o en otros medios hágalo aquí explíquelo aquí gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro en el texto de la justificación de su propia pregunta que presentó por escrito está formulando usted mismo la respuesta

casi todo lo que usted a escrito es cierto es cierto que en mi intervención ante esta cámara

en el debate de política general mi propuesta como lehendakari que se puede resumir en una frase tenemos la oportunidad de actualizar nuestro estatus de autogobierno sobre una base acordada usted ha hecho referencia a una intervención posterior pero usted olvida

en ese debate de política general en respuesta a usted mismo cuando yo me declaraba como nacionalista vasco por ser miembro del partido nacionalista vasco y por lo tanto

miembro del partido nacionalista vasco está claro en todo caso mi planteamiento como lehendakari lo he planteado en el debate de investidura lo he planteado en el debate de política general

en respuesta a su planteamiento es cierto que propuse la constitución de una ponencia en este parlamento y un método de trabajo que asuma los principios

que como lehendakari apuesto porque sea en el foro del parlamento vasco donde los diversos grupos parlamentarios presenten sus iniciativas sus propuestas para este debate y análisis del estatus de autogobierno en lo que yo responda como lehendakari

es evidente que yo estaré en lo que el partido nacionalista vasco esté defendiendo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sí señor lehendakari ya sé que usted es nacionalista y que quiere la independencia eso lo sabemos pero queríamos que nos lo explicara en sede parlamentaria

no en una radio al día siguiente sino en el debate de política general es lo que yo le pedí y usted dijo no queremos contaminar el debate no quiero contaminar el debate no puedo explicar concretamente qué es lo que yo quiero y sin embargo en una radio sí lo hace eso no contamina el debate eso no divide a la población

en todo caso insisto por transparencia creo que es aquí donde usted debe concretar qué es lo que quiere y puesto que usted plantea sus ideas soberanistas en las radios yo le planteo las nuestras en sede parlamentaria que creo que es donde debe hacerse

señor lehendakari es una falacia la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles el censo electoral no se puede fraccionar y hay que respetar la legalidad vigente y los procedimientos democráticos espero que usted

el censo electoral no se puede fraccionar el derecho a decidir es una falacia y la soberanía corresponde al conjunto de los ciudadanos españoles nuestras ideas
claras se las décimos aquí en sede parlamentaria lehendakari gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakariak dauka hitza

que hice referencia a los conceptos de bilateralidad al que antes he aludido también hice referencia a lo que es una propuesta de

por lo tanto también ejerciendo el derecho a decidir el reconocimiento de euskadi como nación en el ámbito internacional la relación también institucional normalizada con comunidades

se lo dije en el debate de política general y hablé también de la posibilidad de relaciones institucionales en el punto de que también vayamos conformando una europa basada en la europa de las

señor maneiro en la ponencia parlamentaria podremos dialogar y debatir sobre los diferentes modelos lo que no me podrá usted negar por lo tanto aludiendo a lo fue mi respuesta a usted en el debate de política general es falta de claridad

el partido nacionalista vasco tal y como usted dice lo que upyd defiende

su propia propuesta está escrita y está recogida en el programa electoral con el que yo me he presenté

el modelo del acuerdo británico escocés al que usted hace referencia señor maneiro

efectivamente una referencia de interés para nosotros es un modelo que habla de transparencia y es un modelo que habla de democracia de bilateralidad

personalmente la validez de estos principios de ese modelo conozco su propuesta señor maneiro usted pretende que las decisiones fundamentales sobre el futuro de euskadi se adopten en españa y nuestra propuesta

en euskadi son dos modelos que tendremos ocasión de debatir y valorar en este parlamento

de alcanzar un acuerdo respetando los principios de transparencia democracia bilateralidad

señora presidenta buenos días señores y señoras parlamentarios miembros del gobierno señor lehendakari es una pregunta la respuesta oral en pleno

lo que yo creo que es un error en el documento del partido nacionalista vasco y del

partido socialista de euskadi que usted ha asumido del que el gobierno ha asumido en el documento firmado

mencionados para conseguir una euskadi más moderna sostenible etcétera figura

inversiones estratégicas para vertebrar territorio cinco en el territorio

cinco en el territorio histórico de gipuzkoa una en el territorio histórico de álava y además mientras en las inversiones que no son discutibles ni discutidas por este parlamentario de los territorios hermanos

prácticos lo que afecta a la inversión alavés a la infraestructura alavesa es

anteriormente ya planteadas y clarificadas está claro que el gobierno vasco ha manifestado su apoyo incondicional a ese acuerdo y ha dicho que lo llevará a la práctica

si esto es un error es decir si esta desproporción este desequilibrio absolutamente clamoroso en relación con las inversiones planteadas en el documento es así

ese documento en cualquier caso le planteamos esta cuestión de cómo valora

presencia del territorio histórico de álava en la relación de inversiones estratégicas que figuren en la adenda del acuerdo firmado entre el pnv

el partido socialista de euskadi es posible que el partido socialista

álava y el partido nacionalista vasco álava no hayan hecho suficientemente los deberes pero en cualquier caso

el acuerdo suscrito entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco tiene dos

y segundo la reactivación económica y del empleo en el ámbito de la reactivación económica de empleo

la internacionalización la innovación la industrialización y la inversión en infraestructuras en este capítulo de infraestructuras

en un anexo el acuerdo pretende la realización de inversiones en infraestructuras importantes no solamente esas algunas de las que aparecen en ese anexo están en marcha son proyectos que ya se están ejecutando derivan de la legislatura anterior

álava tiene en este momento dentro de la planificación en inversión de infraestructuras comprometidos ejecutándose y en fase de ejecución este año y los dos

y se lo voy a explicar tenemos una inversión importantísima

que es la referente a la de una estación de autobuses nueva a la que el gobierno vasco

porque va a originar un transporte más eficaz más eficiente y sostenible para la comunidad autónoma y en especial para los residentes en álava

de la infraestructura del palacio de congresos de vitoria que va a dar actividad y que es un elemento tractor

esencial también para el territorio histórico de álava hay un tercer elemento como es

que tiene una aportación de ocho millónes de euros en los compromisos de este

y hay una infraestructura muy importante de equipamiento público social

como es el centro municipal de salburua que tiene una aportación del gobierno vasco de nueve millónes todo eso está

en el acuerdo de reactivación económica de empleo en el capítulo relativo a las inversiones en infraestructuras del año dos mil trece dos mil catorce y dos mil dieciséis tal como está previsto en el acuerdo con el partido socialista muchas gracias

jarraian barrio jaunak dauka hitza muy bien gracias

esas inversiones que usted me dice también están en otros territorios históricos y en otras ciudades no vamos a ver

a lo que pone un acuerdo y a lo que dice una adenda de un anexo de reactivación económica metro donostialdea euskotren en gipuzkoa variante ferroviaria en ermua hospital de eibar

portugalete bizkaia línea tres del metro de bilbao etorbizi bizkaia regeneración urbana a la bahía de pasajes gipuzkoa nada más y nada menos zumarraga

también se da en los territorios urbanos también se da en bilbao también se da en san sebastián ese tipo de inversiones de las que usted me dice

a corregir los errores y esta adenda es un

y una proporción en relación con las inversiones en álava se lo digo de verdad señor consejero no me ha contestado el lehendakari pero me valen perfectamente sus explicaciones

alavés y del partido socialista de euskadi alavés lo ha habido es clamoroso en esa adenda porque bien se podría hablar en esas inversiones en esa adenda de inversiones que desaparecen por completo

el convenio de obras hidráulicas de regadío y de depuración que es necesario y que está ahí todavía pendiente

de donostia las inversiones logísticas en álava las que no se sabe todavía nada en el hua

gracias señora presindeta señor barrio mire aparte de todo lo que le he dicho de inversiones importantísimas en territorio de álava le voy a poner otro ejemplo esta misma semana hemos sucrito un acuerdo interinstitucional con la diputación de álava que abarca

en una operación financiera específica para álava para infraestructuras hidráulicas para desarrollo rural para carreteras internas y sobre todo también para dotar a álava

de vivienda pública social tenga usted y ponga en valor lo que supone para álava eso nueve millónes en operación financiera y veintiuno millónes del gobierno vasco pero es más

el gobierno vasco el pasado mes de julio el lehendakari suscribió un acuerdo

estratégico de veinte millónes de financiación para la mejora de los servicios de la única ciudad que tiene ese tratamiento en la comunidad autónoma de veinte millónes a cuatro años con una organización de cinco millónes en cada uno de los años y dos últimas consideraciones el gasto territorializado de la comunidad autónoma

es superior en el territorio alavés al coeficiente de aportación que horizontalmente realiza la financiación de las instituciones comunes en todos ellos

el gasto territorializado en álava es un veintidós coma setenta y ocho por ciento del conjunto la inversión un veintidós coma veinticuatro por ciento sabe cuál es coeficiente aportación de álava a las instituciones comunes un dieciséis coma veintitrés por ciento un diferencial de seis puntos se lo digo porque como consejero de hacienda conozco muy bien la realidad gracias

a usted señora mintegi el camino recorrido parece que no les dice nada

subrayar que este pueblo ha avanzado que ha avanzado y de hecho prueba de que ha avanzado es el que ustedes también estén aquí y es por lo que me felicité sabiendo que ustedes podíanestar aquí e iban a estar aquí

desde el gobierno vasco nos avala el camino recorrido hasta la fecha que los pasos que hemos dado durante estos años están documentados los que proponemos ahora están escritos y que es innegable que los pasos que hemos dado también liderados desde el partido nacionalista vasco en la responsabilidad institucional que nos ha correspondido
han hecho que este pueblo vaya alcanzado cotas de soberanía que nunca las había tenido eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna mintegi andrea zurea da hitza

el hecho de que esta coalición esté ahora aquí no es un avance es el reflejo de un retroceso que ha habido y una falta de condiciones democráticas que ha habido y que ahora poco a poco y todavía con muchas deficiencias y con muchas carencias se está empezando a enmendar

beste modu batera esateko de lo que se dice el discurso no llega de la boca a los pies si realmente se hiciera lo que se dice

pero no llega de lo que se dice a los pies de los discursos de un alderdi eguna o de la independetzia que se oye

a los pasos que se va dando después pasos muchas veces que van en contra de todo el ambiente circundante que se pone sordina se pone freno precisamente a una situación de soberanía

un futuro para euskadi desde un proyecto de país compartido hemos propuesto un lugar hemos propuesto un método de trabajo para caminar juntos

dialogar con todos negociar y pactar y nadie va a imponer nada a nadie

esta es la acción política representativa y democrática de un

el tema de la ertzaintza con lo sucedido con amalur mezclando interesadamente a la ertzaintza dentro de lo que es esa reflexión sobre el plan de paz

y lo debe hacer utilizando la fuerza de forma proporcionada

de forma proporcionada usted hace referencia a un lamentable incidente y hemos actuado con rapidez

adoptaremos las medidas disciplinarias oportunas en el caso de que no se haya actuado siguiendo la normativa interna existente en la utilización del material antidisturbios

pero insisto el primer paso señor arzuaga es exigir a eta

verificable esto hemos hecho nosotros y ustedes ustedes en este sentido qué han hecho o qué van a hacer

de quien quiera dar un paso atrás sea quien sea la única respuesta ante un paso atrás es dar dos pasos adelante y los pasos adelante los tienen que dar ustedes

ustedes de ustedes se espera que exijan el desarme inmediato de eta

a que los presos se puedan acoger a los beneficios penitenciarios de ustedes se espera que reconozcan que lo que eta hizo estuvo mal y una lectura crítica del pasado

a hacer esto y hacerlo públicamente en el declaródromo si usted está dispuesto le acompaño inmediatamente a hacerlo me pregunta qué va a hacer el gobierno

legebiltzarkideok egun on guztioi lehendakari usted como yo sabe que euskadi ha sido ejemplar en el compromiso con la cooperación al desarrollo sus ciudadanos siguen siéndolo espero o creemos que su gobierno

de las circunstancias desde el inicio mismo de la presente legislatura los socialistas hemos defendido que los fondos que su gobierno dedique a la cooperación al desarrollo en dos mil trece deberían ser similares en términos relativos al menos a los que dedicó el gobierno del lehendakari lópez en el ejercicio dos mil doce

cámara responsables de su gobierno se manifestaron en sentido absolutamente contrario incluso en el proyecto de presupuestos para dos mil trece que ustedes remitieron a este parlamento

al desarrollo evidenciaban un recorte del cuarenta por ciento respecto a las de dos mil doce el grupo socialistas vascos junto con otros presentamos iniciativas con la intención de evitar

el pasado veinte de junio el pleno de este parlamento aprobó una proposición que instaba

a que en la ejecución presupuestaria del ejercicio dos mil trece se mantuviese un gasto equivalente al menos al cero coma cinco por ciento del total

a la cooperación al desarrollo este apartado en concreto fue aprobado por todos los grupos de este parlamento a excepción del que apoya su gobierno fueron cuarenta y siete votos a favor frente veintiocho en contra por otra parte

por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para dos mil trece en su artículo segundo expresa

que el importe global de la dotación económica destinada a esta convocatoria será de diez millónes de euros teniendo en cuenta que esta cantidad no coincide con el cero coma cinco por ciento previsto en la ejecución presupuestaria del total le formulo la siguiente pregunta cuál es el criterio del gobierno vasco en relación a la adopción de otro tipo de acciones que conlleven el cumplimiento del acuerdo parlamentario de veinte de junio de dos mil trece muchas gracias

señor unzalu sabe usted que en los

sabe usted que me duele esta cuestión en lo que es el esfuerzo que tenemos que hacer y le digo señor unzalu que el gobierno está haciendo el máximo esfuerzo posible para mantener los proyectos de cooperación al desarrollo en una situación de presupuesto prorrogado como es el que tenemos que gestionar le diré en primer lugar que la cantidad inicial con la que se ha dotado la convocatoria a la que usted hacía referencia no supone la totalidad de los recursos económicos

le diré por lo tanto señor unzalu que el gobierno a la vista de las disposiciones económicas y de ese esfuerzo que estamos haciendo en un tema tan sensible que me duele personalmente a mí y al conjunto del gobierno va a incrementar el importe de la cantidad para las subvenciones a los proyectos

un aumento de un veinticinco por ciento respecto a la previsión inicial

todos los proyectos de cooperación del pasado año y que lo vamos a cumplir

y quiero reiterar también que tanto la agencia vasca de cooperación como la coordinadora conocen de primera mano esta situación como usted bien sabe y conocen también como usted bien sabe también nuestro compromiso para el conjunto de la legislatura eskerrik asko

como usted se lo puede imaginar primero ustedes hicieron un recorte del cuarenta por ciento a las partidas de cooperación al desarrollo

departamento se había reducido el cuarenta por ciento

en varias ocasiones a usted y otros representantes de su gobierno no nos parecía lógico

el mismo que por ejemplo que protocolo y con todo el respeto para las personas que se dedican a esta labor dentro de su gobierno por lo tanto ustedes ya tomaron una primera opción que fue no

la cooperación al desarrollo bajo criterios de políticas sociales de políticas

y por ejemplo como digo las asimilaron más a los recortes que ustedes hacían en protocolo por ejemplo por lo tanto

de planteamiento o sea la cooperación al desarrollo la han visto desde otro punto de vista y no como una política social porque

para otras políticas sociales en su proyecto decaído de presupuestos no eran las mismas había políticas sociales que había recorte del siete del nueve del diez en este sin embargo era el cuarenta y esto yo creo que es un problema de fondo y luego hay otra cuestión

pero con esto no cubre ni con mucho lo que le ha dicho este parlamento

el mandato que le ha dado este parlamento por una mayoría absoluta y amplísima yo creo señor lehendakari que están ustedes en dos errores primero en la valoración de la cooperación y luego en no tener en cuenta los mandatos que surgen de este

le he dicho que la convocatoria abierta no supone la totalidad de recursos destinados a la cooperación en este ejercicio no solamente los que dependen

atienda usted a la realidad en su conjunto porque el conjunto del gobierno

y le insisto además de las subvenciones a proyectos con el incremento presupuestario reseñado el gobierno convocará un procedimiento para la concesión de seis becas de especialización además le puedo adelantar que el gobierno va a hacer pública una nueva convocatoria no prevista inicialmente de ayudas a organismos internacionales del sistema de naciones unidas para becar a las personas cooperantes voluntarias que participen en proyectos de desarrollo de dichos organismos internacionales en países empobrecidos

para el desarrollo ha sido financiado en su totalidad por recursos del departamento de educación política lingüística y cultura esto significa que se ha diversificado la fuente financiadora y el programa se ha mantenido entendemos por lo tanto lo que es la cooperación al desarrollo desde una política social

porque además el propio departamento de salud financia con sus propios recursos los costes de la atención sanitaria de la infancia procedente de países en vías de desarrollo nuestro gobierno en su conjunto por lo tanto señor unzalu está comprometido

le pido que reconozca que pese a las evidentes limitaciones presupuestarias y esto es de lo que no podemos escapar este gobierno está haciendo un esfuerzo por mantener un estándar

como siempre ha caracterizado a las instituciones vascas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamabigarren puntua

de esta manera se ha manifestado la comisión europea

se pone de relieve entre otros aspectos que el coste de la energía está aumentando en casi todos los estados miembros y contribuye a la desindustrialización de europa

los costes de producción sobre todo de la energía y las materias primas atraer la inversión simplificar el desempeño diario de la actividad empresarial y mejorar la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas pero en españa

e irlanda así mismo el precio del consumo industrial excede sobradamente el precio medio de la unión europea

los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir los costes de las actividades reguladas acumulándose

un déficit de tarifa las reformas eléctricas llevadas a cabo no acaban de solucionar el problema y el incremento del precio de la energía para resolver el déficit

en empresas con una gran capacidad exportadora y no se puede seguir cargando este déficit sobre algunas empresas que ya no tienen margen para competir ya que eso puede provocar cierres deslocalización de empresas y más paro la industria vasca tiene que seguir siendo el motor de la recuperación económica

ya entre los más altos de europa perjudicaría claramente a la economía de euskadi el peso del sector industrial manufacturero en la economía española es del trece coma tres del pib frente al quince coma tres de media en la unión europea

en euskadi gracias al apoyo continuado durante muchos años del gobierno vasco

es intensiva en consumo de energía porque buena parte del tejido industrial vasco

como son las del acero automoción y bienes de equipo en estos momentos

y no podemos permitir que la reforma eléctrica lastre su futuro y lo aboque al cierre

es necesario tomar medidas para paliar el impacto negativo de la reforma eléctrica en los sectores industriales en los que por su intensidad de consumo energético son los más afectados

sobre los propósitos en relación con la política energética eskerrik asko eskerrik asko carro jauna erantzuteko jaurlaritzaren

en los que se basa la reforma actual que lejos

se diseña con el único objetivo de responder a una deuda tarifaria un déficit tarifario que arranca en el año dos mil cinco y que año tras año en el dos mil trece acumula hasta un total de veintiséis mil millónes de euros es decir una política energética

empresas sino para responder a un déficit económico

hacienda y desde la política económica este año el ministerio de hacienda se encuentra en la necesidad por tanto de responder a ese déficit y de reducir en cuatro mil quinientos millónes de euros ese concepto cómo lo soluciona pues muy sencillo

elimina primas y bonificaciones a energías hasta el momento suprabonificadas energías renovables como la eólica y la fotovoltaica la solar de cualquier otras características

carga una parte importante sobre los propios consumidores y hace que nuestras empresas las empresas en su conjunto asuman un coste de novecientos millónes de euros no olvidemos como decía el señor carro que en este caso euskadi aporta una buena parte de esos novecientos millónes de euros cuando por ejemplo en el sector de la siderurgia

se encuentran en euskadi es una decisión en términos contables bajo criterios estrictamente haciendísticos como les comentaba que desoye cualquier criterio lógico que tenga que ver con una política industrial seria

a las políticas y a las recomendaciones de la unión europea y una decisión que nos aleja de otras políticas industriales tan cercanas como la de francia y alemania

y que provocan serias pérdidas de competitividad de nuestras empresas en conclusión un gobierno español

pero que ha demostrado además carecer de política energética y lo peor de todo con unos cálculos y aquí prefiero ser prudente y calificarlo como de momento solamente equivocados que han provocado una enorme preocupación en el ámbito de la industria en euskadi en esta consejera y en este gobierno el ministerio de industria preveía un incremento de las tarifas energéticas para una empresa de alrededor de un siete coma cinco por ciento

pues bien en euskadi este incremento medio será superior al veinte por ciento y habiendo empresas evidentemente si como media llegamos al veinte hay empresas

justamente lo contrario de lo que la industria vasca merecía en este momento

al que difícilmente podrán atender con la fortaleza necesaria

no lo merecen no es el momento y porque sino es bueno para la industria desde luego no es bueno para euskadi aurrera egingo dut

y vamos a seguir apoyándola desde el grupo nacionalista vasco como siempre lo hemos hecho cuente con nosotros consejera para remar juntos y sacar adelante nuestra industria y nuestro país hemos visto consejera

que agrupa empresarios patronales y cámaras de comercio para analizar la situación y los efectos que tendrán las modificaciones que prepara el gobierno central en el sector eléctrico nos podía adelantar qué medidas o acciones ha puesto en marcha o tiene pensado realizar

como comentaba el pasado dieciocho de diciembre mantuve una reunión con el ministro

y les puse y advertí el escenario tan complicado al que se afrontaba

no solo las pequeñas y medianas industrial como comentaba sino también

le entregué el estudio realizado por estas empresas a las que antes me he referido

atendiendo a todos los aspectos que le mencionábamos en ese informe además recogíamos una serie de sugerencias para mejorar esta reforma energética y para paliar los efectos que se producían en la industria vasca esta serie de reclamaciones técnicas

que sean atendidas estamos en este momento a la espera de esa respuesta centramos nuestras reclamaciones sobre todo en una serie de aspectos que les voy a comentar en lo que se refiere a dar seguridad retributiva a la cogeneración industrial

es una parte importante de la competitividad de muchos procesos realmente demandadores de energía

centrales de cogeneración en euskadi es relativamente muchísimo más alto que en cualquier punto del estado por tanto esta reforma incide especialmente en euskadi por otra parte

y no como la realmente restrictiva que tenemos en este momento y además pedíamos que se analizaran modelos europeos en los que existen excepciones fiscales o bonificaciones al consumo energético en determinados

industriales que se consideran prioritarios para cada uno de los países y poníamos como ejemplo francia y alemania por considerarlos cercanos y posibles dentro de la unión europea

por la competencia se trata de cuestiones que con voluntad política sin ninguna duda el gobierno de rajoy puede cometer el gobierno del señor rajoy solo necesita voluntad política para cometer todas estas mejoras

públicamente un empresario vasco solamente hace falta aplicar un poco de sentido común un poco de sentido

de mejora de la situación económica mientras esto se atiende mientras

regulatoria y ante la previsión de que esta reforma avance de forma arrolladora porque ya nos tienen acostumbrados últimamente este pasado miércoles

algunas empresas afectadas es decir tratando de llegar al máximo

y nos hemos comprometido a trabajar de forma conjunta para trabajar en esa respuesta que palie los sobrecostes de la reforma y podamos llegar a todos los ámbitos en los que se trata esta reforma en la tarde del miércoles impulsamos además dos iniciativas muy concretas iniciar un proceso de análisis

un informe detallado del impacto de la reforma en todos los aspectos que les hemos comentado

hemos habilitado desde el ente vasco de la energía un servicio de asesoramiento técnico para interpretar y optimizar esa factura eléctrica que está llegando en este momento

donde difícilmente ese asesoramiento puede estar disponible para todas y cada una de nuestras empresas gauzak horrela gure esku dagoen guztia egingo dugula